gracias señora presidenta buenas tardes de nuevo a todos señorías

lo único razonable es acatar y actuar en consecuencia pero también se puede retorcer la norma para seguir actuando en contra de la ley incluso lanzar campañas de desprestigio de los jueces en cuanto a su crédito

pero en el caso que nos ocupa el tribunal superior de justicia del país vasco dictó la anulación del requisito de perfil lingüístico en la ope de dos mil diecisiete para la policía local de irún al considerar discriminatoria la exigencia de conocimientos del euskera para optar a las plazas a concurso

al derecho de todos los ciudadanos a optar a los empleos públicos sin duda una sentencia muy contundente y que no invita a interpretaciones diferentes es más

que no es necesario que todos los agentes de la policía municipal conozcan la lengua vasca para garantizar a los ciudadanos su derecho a relacionarse con la administración en euskera y añade que sería suficiente con que uno de los integrantes de cada pareja

para garantizar ese derecho a la ciudadanía pero lejos de acatarla hoy podemos nos plantea reajustar la normativa en vigor para evitar el necesario control judicial y revisar la existente para ajustarla a una realidad que cada cual pinta como mejor le conviene

en tres de cada cuatro hogares lo que de respaldarse la propuesta de podemos nos debería llevar a rebajar las exigencias del perfil lingüístico en euskera

es más imagino que los partidos del gobierno no se refieren a esa realidad cuando defienden que la lengua vasca ocupe el lugar que le corresponde en el día a día de la ciudadanía

para seguir imponiendo un proceso de normalización del uso del euskera que hay que recordar que también ha llegado al tribunal constitucional de la mano en este caso del tribunal superior de justicia del país vasco todo gracias a un recurso que interpuso vox

sostienen en relación con el decreto de normalización del euskera que desarrolla la ley vasca que regula además las relaciones de trabajadores y ciudadanos con las entidades locales

o primacía de una de ellas condiciones estas que de no respetarse afectan al acceso y ejercicio de funciones de representación de los ciudadanos pero insisten en imponer el euskera en el sistema educativo en las ofertas públicas de empleo incluso quieren imponerlo en las empresas

en este punto un tremendo despropósito que podemos nos pretenda colar en su propuesta inicial

qué es eso de ampliar el crédito horario para el estudio del euskera en la empresa privada porque supone una injerencia de lo público en el ámbito exclusivamente privado porque además supone un intento de imponer su criterio allí donde no tienen competencias para hacerlo es decir en el sector privado

este tipo de ofrendas que ustedes quieren hacer el empresario quiera o no pregunto dicho esto es de justicia y nunca mejor dicho

sea cual sea la administración que la convoque para evitar la discriminación del castellano con respecto al euskera para acabar de una vez por todas con la discriminación de las personas
según sea su mayor o menor conocimiento de la lengua vasca a la vista de las recientes sentencias y autos creo que es una cuestión de justicia muchas gracias eskerrik asko

gracias presidenta lehendakari señorías buenas tardes

señora gorrotxategi nosotros mi grupo el grupo popular ciudadanos no comparte

que se refiere básicamente a las consecuencias o al devenir jurídico de la sentencia de cuatro de mayo la de cuatro de mayo no es de trece de mayo de cuatro de mayo es

la tengo aquí delante y pone cuatro de mayo de dos mil uno

respuesta a la proposición no de ley que nos plantea usted

de la sentencia y de sus fundamentos de derecho fundamentalmente del fundamento número cinco no es

es un problema de realidad lingüística estamos donde estamos vivimos donde vivimos y sabemos el euskera los que lo saben o los que no lo sabemos

hay una realidad en muchos sitios y hay una

que preservan derechos en este caso el derecho de acceso

y el derecho a no ser discriminado en relación con ese derecho

por eso es una sentencia con un contenido muy razonable porque habla de derechos para los que saben

que es muy interesante leerla y con una explicación sencilla pero contundente la sentencia en materia lingüística

y eso es el elemento fundamental y usted está planteando una reflexión de avanzar en aspectos de limitar

euskera a la vista de cómo reacciona usted en relación con esta sentencia y la pretensión

oferta pública de empleo de la policía municipal de irún era y se ve lo perfectamente lógica y adecuada a las leyes la sentencia dice que nada se opone a que los poderes públicos prescriban en el ámbito de sus respectivas competencias el conocimiento de ambas lenguas

o que en general se considere como un mérito entre otros el nivel de conocimiento de las mismas bien entendido todo ello

ha de hacerse dentro del necesario respeto a los artículos catorce y veintitrés de la constitución española es que la tenemos para eso la tenemos como garantía y sin que en la aplicación del precepto legal en cuestión

en definitiva el empleo del euskera implica la provisión de los medios necesarios entre ellos la presencia de personal vascoparlante tanto en la administración de la comunidad autónoma vasca como en la periférica del estado

setenta y seis barra mil novecientos ochenta y tres como modo de garantizar el derecho a usarla por parte de los ciudadanos de la respectiva comunidad y en relación con la previsión expresa que con respecto a este artículo hace la disposición adicional tercera o sea que tiene que haber en las oposiciones tiene que haber garantía para que la población

que es lo fundamental el decreto legislativo uno barra dos mil veinte

se adecuará en cuanto a los niveles de competencia lingüística en euskera exigibles y a la valoración que hubiera de otorgarse el conocimiento de dicha lengua las previsiones establecidas en la ley seis barra ochenta y nueve de la función pública pues bien esta ley en su artículo noventa y siete punto siete establece que los criterios de aplicación preceptiva

para los puestos de trabajo existentes en cada administración sin diferenciación en razón del cuerpo escala nivel o grupo de titulación al que corresponde la función es decir vemos cómo la legislación reguladora en esta materia trata de encontrar

entre el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la administración en euskera y el derecho de los castellanohablantes a acceder a los cargos públicos y eso está muy claro

eso se fundamenta en la legislación que usted quiere revisar absolutamente y en la que tenemos está bien claro que la sentencia sigue diciendo que a partir de ahí

cómo se han producido los acontecimientos dice que el volumen de la población que en el municipio de irún utiliza el euskera

que así resulta de un informe realizado a instancias de la propia administración local

por el reclamante y por la administración es que la ha hecho la administración local la municipal ha hecho ese estudio y la lengua vehicular es ocho por ciento no llega o sea que

efectivamente y no será la revisión completa de la ley y bueno y sigue hablando la sentencia dice muchas más cosas está bien claro que he recogido algunas de las cuestiones no es muy larga y está

y yo le digo que mire hay que acatar las sentencias

yo creo que usted la acata o que quiere revisar muchas cuestiones

leer las sentencias y corregir las disfunciones y las disfunciones no van siempre en el mismo sentido

mismo sentido y en este caso vemos que la discriminación es de alguien que no sabía euskera en relación con esta cuestión o sea y

para esto y para estas cuestiones en relación con la discriminación en este caso pues no es necesario señora gorrotxategi en su proposición no de ley quiere revisar toda la normativa es decir hacer tres o cuatro planes estratégicos dos o tres planes estratégicos nos propone revisar la normativa vamos a ver es una cuestión de hacer las cosas bien

de analizar la situación y de hacer las cosas bien y de que podamos participar todos en los procesos de acceso a la función pública

analizando la realidad con normalidad como marcan las leyes además por eso hay este tipo de sentencias una sentencia tan clara y concreta

usted quiere hacer una revolución normativa estratégica

en este momento en el sentido de profundizar además en la discriminación porque yo creo que lo que usted ha sacado como conclusión de la sentencia

usted yo creo que quiere profundizar en la discriminación y que yo supongo que querrá eliminar con su actuación eliminar o limitar garantías a los que no conozcan el euskera en el acceso a la función pública es que yo creo que quiere eso persigue eso no no

lo dice la ley eso lo dice la constitución o sea que en ese sentido solo se

podamos apoyar si se quiere discriminar a los que no saben euskera

el ocho por ciento o la lengua vehicular es el ocho por ciento de la población o sea que está así

por eso por mucha legislación por muchas normas por muchos planes que usted nos proponga nada puede ser discriminatorio e ir contra la normativa constitucional bien nosotros hemos presentado

así en mil novecientos ochenta y dos los socialistas votamos a favor de la ley de normalización del euskera con el deseo de que fuese y leo literalmente el diario de sesiones

una ley que prosiguiese un camino de recuperación de nuestra lengua ancestral con acuerdos en lo fundamental porque para la salvación del euskera es necesario este acuerdo mayoritario para no convertir la lengua vasca en un instrumento ideológico de un grupo que sirve como arma arrojadiza frente a otro sector social y terminábamos

del veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y dos diciendo que es necesario ilusionar a la mayor parte del pueblo vasco que este objetivo es de todos y no de unos pocos

lo teníamos claro hace cuarenta años y lo seguimos teniendo claro hoy el euskera es patrimonio de todo el pueblo vasco ni es de unos ni está en contra de otros ni es un monopolio del nacionalismo vasco ni ha de ser arma arrojadiza del nacionalismo español

el euskera es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección eta horrela nire hitzaldiaren bigarren puntura iritsi nahi dut euskara

nahiz eta gizartean adin horretako ez euskaldunen kolektiboa ehuneko hamaikakoa baino ez izan nos encontramos pues ante un tema de gran complejidad y que no puede ser tratado con ligereza el euskera es hoy en día un factor de empleabilidad y no solo en el sector público tenemos que vigilar con especial atención para evitar que el euskera se convierta en un elemento más de la brecha laboral programas formativos como los que ha lanzado lanbide

van a ser claves para hacer del euskera una oportunidad más en la búsqueda de empleo no podemos olvidar que no solo se trata de derechos lingüísticos

quizá haya llegado el momento de reconocer que hemos podido confundir los objetivos porque una cosa es garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y otra muy distinta la de lograr la euskaldunización de la administración vasca o de la ciudadanía en general

quizá haya quien se haya sentido tentado de usar la primera para lograr la segunda

la razón de cierta frustración política y confusión social asumamos que a cada uno de estos objetivos es decir el de garantizar los derechos lingüísticos y el de euskaldunizar la sociedad se llega por caminos totalmente diferentes

no son ni deben ser unificados no confundamos a la ciudadanía y sobre todo no nos confundamos nosotros mismos

talde bati edo besteari interesatzen zaizkion terminoetan zentratu eztabaida el euskera ni es una imposición de una parte de la sociedad

de obligado conocimiento para formar parte de ninguna comunidad

han sido años muy difíciles posiblemente todos los grupos tengamos que hacer un examen de conciencia sobre el uso político que hemos hecho de esta cuestión desapasionadamente

y que tenemos que ser capaces de custodiarlo y transmitirlo acrecentado a las generaciones venideras pero digámosle también que se acerquen a él sin complejos sin prejuicios el euskera no les va a hacer ni mejores vascos ni peores españoles

su forma de ver y enfrentarse a este mundo tan complejo y globalizado que nos está tocando vivir

asimismo los españoles tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalan

las leyes de las que nos hemos dotado empezando por este artículo seis del estatuto de gernika siguiendo por los artículos cinco punto dos y cinco punto tres de la ley de normalización del uso del euskera que desarrolla aquella amén de otras disposiciones de menor rango que desarrollan las anteriores y que conforman nuestro ordenamiento jurídico

derechos de los que las administraciones públicas son garantes en el ámbito de toda la comunidad autónoma de euskadi a fin de que esos derechos sean efectivos y reales

siendo eso en este caso el requisito que establece la ley y teniendo en cuenta además que en los últimos cuarenta años el número de gente que conocen la lengua vasca creció en trescientos mil personas

potencialmente creciente y eso no constituye ninguna discriminación hacia quién no conoce el euskera porque y me dirijo a los numerosos juristas que hay en esta cámara cuál es aquí el bien jurídico protegido

los derechos lingüísticos fundamentales de los vascos en cuanto al uso del euskera reconocidos en el artículo cinco punto dos de la ley diez barra mil novecientos ochenta y dos de veinticuatro de noviembre básica

eskerrik asko berriz ere señor carmelo barrio

la posible discriminación es el objeto central de todo este debate

del principio de igualdad el principio de igualdad que es el catalizador por cierto de la consecución de la justicia

qué es el secreto del principio de igualdad tratar igual lo que es igual tratar desigual lo que es desigual porque si no

la constitución en el artículo nueve que recoge el principio de igualdad quien dice que los poderes públicos están obligados a remover los obstáculos en el caso de que existan desigualdades y cuando trasladamos el principio de igualdad y de no discriminación y la necesidad de remover los obstáculos para que la igualdad sea real y efectiva cuando lo trasladamos al debate de política lingüística cuando lo trasladamos a una situación de

lingüística desigual en este caso lo que el principio de igualdad demanda es un acto un trato favorable

más débil en este caso el euskera a quién corresponde hacer ese equilibrio porque es verdad que hay que hacer un equilibrio entre derechos lingüísticos y realidad lingüística a quién le corresponde hacer este equilibrio al legislador desde luego

no a un juez que además no es que dé una sentencia que va más allá de la ley es que es una sentencia

porque resulta que acoge para determinar cuántos

de la lengua y no como dice la ley con el conocimiento de la lengua y este es el factor que en todo caso debe ser tenido en cuenta

ciertamente si el uso de la lengua en un lugar en el que el conocimiento de la lengua es muy superior al de su uso no se está hablando precisamente de una debilidad de una debilidad que tiene una de las lenguas nuestra lengua una de nuestras lenguas oficiales

y queremos protegerla entonces este dato nos tendría que preocupar muchísimo

de nuestra proposición no de ley precisamente precisamente y en relación con esto facilitar justamente el aprendizaje de la lengua vasca a quien no la conoce sin merma de los derechos de nadie ese es el objetivo principal

bueno muy brevemente yo haría una pregunta a nivel general a todos los miembros de esta cámara

creen que los recursos económicos e institucionales que se dedican al euskera son escasos porque yo creo que es un amplio aporte económico el que se está dedicando al impulso y la implantación del euskera con pésimos resultados como estamos observando el euskera está claro que no puede generar discriminación

a fecha de hoy el que quiere aprender euskera tiene todo el apoyo de la administración todo el apoyo tanto económico como personal lo que no es de recibo es la imposición atacando además a uno de los puntos más débiles de nuestra sociedad el trabajo el pan de muchas de nuestras familias eso no es de recibo claro que es discriminatorio y les voy a poner además un ejemplo de pie de calle

repito treinta y cinco años un buen médico o médica porque los años que ha prestado al servicio de salud vasco

curiosamente se va a jubilar sin plaza fija curioso saben por qué porque no tiene el perfil lingüístico del euskera esto no es una discriminación

no somos juristas señor urrutia claro que no ni tampoco lo pretendemos ni lo vamos a pretender tan solo aceptamos y acatamos las sentencias de los que sí que son juristas muchas gracias

que ha tratado de descalificar la sentencia y ha hablado de un trato favorable al euskera lo hay señora gorrotxategi lo hay no hay más que ver la normativa

somos testigos de ello en este parlamento durante todos estos años

pero esa normativa no es ilimitada el trato favorable no es ilimitado y a veces choca con algo la aplicación de determinados usos o determinadas disposiciones en este caso administrativas choca con algo

la puede decir que algo ha chocado en esa normativa en esa aplicación y eso es lo que ha pasado con esa normalidad yo creo que hay que darle esa normalidad

y sobre todo en este ámbito de lo lingüístico se reacciona de esta manera que usted ha hecho tratando de revisar toda la normativa yo creo que no es así yo creo que hay que asumir esta cuestión con normalidad señora ubera usted haga que el derecho a ser funcionario no es un derecho mire

la constitución consagra el derecho fundamental al acceso a la función pública en condiciones de igualdad veintitres punto dos y eso es lo que hay o sea no me diga usted que no es un derecho porque es un derecho que lo consagra

las características de todo esto quiénes son juristas bueno la sentencia es muy clara vemos cómo la legislación reguladora de esta materia además es que la sentencia habla de la legislación reguladora

y el derecho en ese derecho fundamental de los castellanohablantes a acceder a los cargos públicos

y eso es lo que está haciendo esta sentencia pero con normalidad viendo la realidad sociolingüística o sea que en ese sentido yo creo que

tranquilamente esas oposiciones y hacer que las cosas vayan bien y que pueda haber gente castellanoparlante que se presente a la oposición de policía municipal

si es apto y si reúne las condiciones o sea y que no

que hay determinadas cuestiones que tienen que ver con los perfiles que no están bien concebidas de cara a garantizar eso que tendría que ser una no discriminación y eso está claro y por último nosotros no podemos apoyar

que es en relación cuando un grupo trata de descalificar una sentencia que es decir como punto que se respeta las sentencias de los tribunales eso no lo dice la enmienda

los grupos que apoyan al gobierno eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak alonso jauna zurea da hitza

señor barrio respetando el ordenamiento jurídico vigente lo dice la enmienda que hemos presentado pero bueno

yo creo que esta iniciativa tenía dos errores

primera presentarla en el contexto de la sentencia envolver con el paquete de la sentencia lo que ha hecho que quienes no han querido entrar en el debate pues hayan echado balones fuera

incluso glosas a la misma sin haber entrado en el profundo

yo desde luego le agradezco que lo haya traído aquí y la segunda parte si me lo permite de alguna forma peca de ambiciosa decía un profesor mío

y al final esa necesidad o ese deseo de concretar concretar

desde luego a mi grupo de poder llegar a una transaccional estando de acuerdo como estamos en buena parte de todo lo que se dice estamos totalmente de acuerdo pues por ejemplo en la necesidad de ir hacia una hacia una creatividad en la formación del euskera

en la necesidad de dar cobertura a los trabajadores es verdad que cualquier intento de euskaldunización en las empresas privadas tiene que pasar obligatoriamente por una cobertura por parte de la administración

ahí habrá que trabajar sabe usted que tenemos una propuesta no de ley presentada por la señora ubera que en algún momento me imagino acabaremos debatiendo en la comisión que va un poco

también es verdad que tenemos que reflexionar muy profundamente sobre todo el sistema de los perfiles lingüísticos

con el belarriprest o con la necesidad de buscar perfiles mixtos porque obviamente en la infinidad de la administración pública hay un montón de relaciones con la ciudadanía que no exigen obligatoriamente un conocimiento casi filológico del euskera

de revisar el decreto estamos por tanto de acuerdo pero creemos y en esto fíjese que estoy de acuerdo con la señora ubera cuando ha dicho que posiblemente esta iniciativa debiera de ser cinco o seis iniciativas diferentes enriqueciendo el debate de cada uno de estas cuestiones yo creo que pudiendo profundizar

arrastrando al debate en cada una de estas cuestiones a todos los grupos no evitando que se nos escapen que si sentencia para arriba que si sentencia para abajo y entonces

agradecer tanto su esfuerzo como el del señor angulo por intentar hasta el último minuto

tiempo de seguir discutiendo sobre una cuestión que al menos si algo ha dejado en evidencia este debate es que nos preocupa y nos ocupa a buena parte de este arco parlamentario nada más muchas gracias

otra cosa es que pueda manifestar mi desacuerdo con la misma y expresamente se manifiesta el respeto al ordenamiento jurídico en nuestra enmienda creo que no se la ha leído y yo estoy de acuerdo en que en materia lingüística no puede haber discriminación

pero si es que esto es muy sencillo todos conocemos la realidad en la que vivimos quién es el fuerte y quién es el débil

desde cuándo el chico se ha comido al grande luego

estamos hablando de un derecho y el derecho que tienen los trabajadores de trabajar en la administración pública sí pero es que la administración pública tiene que ser garante y lo dice expresamente en nuestro ordenamiento jurídico

de esos derechos que se reconocen esto es muy sencillo en esta casa tenemos un buen cuerpo de traductores

ímprobo seguramente a nivel de euskadi puede haber profesionales de la traducción que sepan incluso

que el que más lenguas sabe de entre los traductores del parlamento pero nosotros necesitamos precisamente quienes sepan euskera porque aquí vienen ciudadanos en calidad de parlamentarios que tienen todo el derecho del mundo a realizar sus intervenciones en euskera y si no tuviéramos

que saben euskera pues probablemente muchos de nosotros no podríamos intervenir como habitualmente lo hacemos es decir eso discrimina

no pero es un requisito importante es el requisito

para poder materializar los derechos a la que los ciudadanos vascos tienen derecho gorrotxategi andrea lehen zatian esaten zenuen ados zeundela nirekin

las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con

la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de españa es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección nik ez dut konstituzioa

nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua la pregunta es a quién a quiénes se discrimina por razón de la lengua

gracias presidenta arratsalde on señorías bien como saben la comarca de debabarrena singularizada históricamente por su carácter

por su notable grado de bienestar socioeconómico viene sufriendo desde hace ya varios años un proceso de pérdida poblacional deterioro urbano y descenso de posiciones en la capacidad

en su bienestar económico y social la crisis de dos mil ocho manifestó con rotundidad esta situación y se ha agravado de manera significativa debido a la pandemia y hoy ha hecho aflorar debilidades del territorio en especial

en lo territorial y social debabarrena ocupa un lugar central en la comunidad autónoma vasca equidistante de las tres capitales vascas

diferentes que se sitúan alejados de los núcleos metropolitanos que tanto bilbao como donostia se han ido conformando con sus estrategias

no por falta de comunicaciones señorías sino por el mismo modelo de desarrollo que en las capitales vascas llevan desde hace tiempo realizando

metropolitana que crece de forma concéntrica y en donostia con la actuación del metro de donostialdea se configura

hasta zarautz pero dejará de nuevo al margen nuestra comarca el punto más lejano en ambos casos es debabarrena además también la creación de la eurociudad vasca

aleja también más la posibilidad de la influencia metropolitana hacia el bajo deba somos una comarca sujeta a peajes y eso significa que somos menos competitivos

la realidad económica centrifuga hacia las capitales vascas conformando polos de atracción de inversión y de residencia y de desarrollo que desequilibran o mejor dicho dicho con claridad limitan muy importantemente nuestra posibilidad de competencia en definitiva debabarrena es una comarca sometida a la influencia urbana cruzada de las tres capitales vascas

comunicada emprendedora y con seguridad

oportunidades en su posicionamiento estratégico respecto a las mismas por eso es

y requiere de políticas de equilibrio territorial que las administraciones

es clave configurar un espacio más atractivo en cada municipio

y sobre todo su complicada orografía han contribuido

muy poco amable con una densidad de viviendas muy alta y con muchos edificios industriales en casco urbano es por lo tanto prioritario intervenir

barrios vulnerables zonas congestionadas como decía y envejecidas

y con muchos edificios de más de cincuenta años y con una gran ocupación del suelo por número importante de edificios industriales hay que afirmar

y hacer ciudades y pueblos más amables pueblos pensados para las personas

esas denominadas ciudad taller aun así el esfuerzo no puede ser unilateral porque seguimos contando con muchísimas dificultades por ejemplo hay infraestructuras viarias

y principales focos de contaminación tanto acústica como por ejemplo atmosférica hay una falta de conexión peatonal ciclista

importantes avances en los últimos años también hay una falta de conexión de los núcleos urbanos con el medio rural

establecer medidas que ayuden a mitigar los efectos de las inundaciones que es el principal riesgo ambiental de nuestra comarca si bien el río deba y sus afluentes

sin estar completado el saneamiento integral de la cuenca baja del río

energética de la comarca por una falta de centros de generación de energía y destaca por eso también una escasa implantación de las energías renovables esto hace señorías que nuestros municipios pierdan atractivo y por lo tanto pierdan también población debabarrena tradicionalmente ha sido una comarca con un marcado carácter industrial lo saben

como el empleo generado por este sector de la actividad económica ha sido un ejemplo de emprendizaje y un pulmón económico para euskadi

dos mil ocho dos mil catorce y la nueva crisis de la pandemia han impactado fuertemente en las empresas y han supuesto la desaparición de una parte significativa

esta destrucción en la mayor parte de los casos ha sido debida

forma sutil casi inadvertida han ido desapareciendo y con ello está desapareciendo también un

en definitiva aparte del efecto de la pandemia en el ámbito

por un lado el necesario proceso de regeneración del tejido industrial y por otro la atracción de inversiones y proyectos de impacto

territorial que antes les comentaba oportunidades hay

más lejos en cuanto al sector servicios se refiere también la crisis ha incidido de manera dura y en lo referente al destino turístico

donde se aglutina turismo gastronómico cultural deportivo etcétera

elementos diferenciadores es el geoparque de la costa vasca al que pertenecen dos de los municipios

concretamente deba y mutriku la mayoría de los negocios existentes en este entorno son de carácter familiar y

en lo social y esto es muy importante se está produciendo un serio problema demográfico una paulatina pérdida de población

y la tasa de ese envejecimiento es muy elevada

para sustituir a las personas en las actividades económicas de las empresas de la comarca el índice de reemplazo señorías en debabarrena es inferior al mínimo necesario

con unas características muy específicas las mujeres suponen la mayoría de las personas en desempleo

hay un porcentaje muy importante que no tiene ninguna cualificación profesional acreditada y el desempleo afecta sobre todo al sector servicios pero últimamente se ha incrementado

y el desempleo de jóvenes menores es también muy importante todos estos datos señoría

los datos numéricos que constituirán parte de lo que se supone aportaremos

y abordarlos con más detalle en la ponencia que hoy acordamos crear en definitiva señorías los socialistas aspiramos

esa euskadi más cohesionada más igualitaria más justa más competitiva y por eso tenemos claro meridianamente claro que debabarrena no puede ser

es un nexo de unión de nuestro país y supone un vertebrador de nuestra comunidad inestimable el esfuerzo de los ayuntamientos insisto es indudable pero sin unas instituciones supralocales

no será posible tenemos mucho trabajo por delante y yo creo que lo que toca es ya que estamos hablando de esto fundamentalmente es ponernos

no sin antes agradecer a eh bildu su aportación y la firma de esta enmienda transaccional que vamos a aprobar

aldatzea ere lortu beharko dugu porque por medio de esta ponencia tenemos la obligación de dar respuesta a los retos del siglo veintiuno

que no se limite a una pedrea presupuestaria el gobierno vasco y las diputaciones deben de fomentar las comarcas ya que hoy en día

esto no hace más que reforzar a las ciudades en detrimento de las comarcas

muchas de ellas terminan en manos de fondos buitres y en manos de que no tiene ningún escrúpulo hacia nosotros hacia nuestro país hacia nuestra comarca

horrela dio tras estos datos se esconde una realidad económica centrípeta hacia las capitales vascas conformándose en dos polos de atracción de inversión

en este parlamento pongamos la lupa sobre una de las comarcas más desfavorecidas nos parece que siempre es bueno y esperemos que esto

ya puedo anunciar de entrada que votaremos a favor de esta propuesta pero sí quiero aprovechar la oportunidad para decir algunas cosas la primera de ellas es que creemos que esto

de un listado de todas las comarcas de euskadi ordenadas en función de un conjunto de indicadores solventes o por lo menos consensuados eso no lo tenemos en primer lugar tenemos el problema de que tengo muy pocos datos por comarcas casi todos vienen por provincias o por pueblos o por municipios se trata de evitar que la elección de las comarcas

o no sé o de otro tipo y que no sé si es muy transparente porque efectivamente ahora se ha propuesto esta comarca está bien seguro que le hace falta repito no lo voy a poner en cuestión

no lo sé todo depende como siempre de los indicadores en los que uno se fije y

aunque no sé para qué contásemos algunos datos significativos es que en la propuesta que se ha hecho hoy no hay ni una sola línea que justifique

que tienen situaciones similares y eso puede hacer que vecinos de otras comarcas

o sentirse un poco abandonados no sé por ejemplo si utilizamos como indicador la tasa de desempleo

un tres coma cuatro por ciento en el primer trimestre mientras que el conjunto de euskadi subió un uno coma seis por ciento eso significa que no hace falta

seguramente sí es decir hará falta y vendrá bien sin duda alguna pero como siempre depende de los indicadores en los que te fijes para que la prioridad sea antes una que otra

hemos descrito la situación de la comarca prácticamente si verdaderamente

cuáles son los objetivos la ponencia tampoco va a resultar muy útil y esa es mi segunda aportación

también consideramos que antes de iniciar ponencias nuevas sería

que hiciesemos una evaluación previa del resultado de las ponencias anteriores de cara a corregir las cosas que hayan podido funcionar mal y potenciar

de que ponencias anteriores no han logrado el objetivo de reactivar las comarcas en las que se han centrado

los déficits estructurales que se veían se siguen manteniendo es decir creemos que hay que hacerlo pero repito creemos que hay que hacerlo bien y

en esta idea desde el punto de vista de funcionamiento interno de las ponencias

estamos terminando como ya se ha dicho los trabajos de la ponencia de la comarca de ayala

y creo que ha sido debido a la cantidad de comparecencias que se han realizado

cuarenta exactamente pero mi sensación particular que me he tragado casi todas es que de las cuarenta apenas la mitad han resultado realmente útiles para de cara a las conclusiones que hemos obtenido y es que el tema de las comparecencias

desde mi punto de vista ha degenerado sustancialmente de forma que lo que en principio estaba previsto

de agentes alguno de ellos sin ninguna representación y otros defendiendo intereses puramente partidistas

y mucho dinero a los contribuyentes y si las ponencias lo que van a ser es un trámite burocrático sin objetivos sin criterios claros y

podíamos ahorrarnos tiempo y dinero y directamente hacer planes de desarrollo que

y ahorrarnos todo ese tiempo creo que ahora es una buena oportunidad para que este tema vuelva a recuperar sus objetivos y la dimensión razonable que nunca

para que la ponencia si se hace consiga sus objetivos en un tiempo razonable y con conclusiones que sean eficaces y repito de acuerdo en constituir la ponencia pero insistiendo en la necesidad de racionalizar la elección de la comarca

ha parecido desde luego mi grupo que no es proponente ni enmendante de esta

la va a defender va a defender el acuerdo al que han llegado ustedes mi grupo algunas de las cosas por las que se ha caracterizado en este parlamento

es por defender que este tipo de herramientas parlamentarias este tipo de ponencias pueden ser útiles otra cosa es que los resultados luego finalmente

y puedan finalmente ser eficaces o no de cara a lo que persiguen y en eso sí estaría de acuerdo con usted

siempre vamos a estar en este tipo de iniciativas yo creo que en este caso la elección de debabarrena como en otras ocasiones han sido o se han citado aquí ezkerraldea oarsoaldea creo que no responden

estoy seguro de que también los partidos políticos tienen intereses concretos a la hora de traerlas a este parlamento parte del juego político pero creo que estamos hablando de comarcas que

una serie de consecuencias de la crisis pero no solo de la crisis de esta y la anterior lo suficientemente agudas como para que se tengan en cuenta a la hora de realizar este tipo de ponencias y decir que sí a este tipo de ponencias al menos por parte de nuestra coalición yo

creo que sí marca unos objetivos para la ponencia yo en este texto veo que se habla de hacer una reflexión profunda sobre las necesidades de la comarca

nosotros estamos de acuerdo es verdad que podríamos decir que sería insuficiente si el único objetivo sería hacer esa reflexión profunda pero bueno

que hay aquí firmado incluye el diseño de un plan estratégico de reactivación comarcal donde entendemos y yo desde luego no voy a adelantar la posición de mi grupo aunque en muchas cuestiones pues es conocida pero se han hablado aquí de los diferentes ámbitos

infraestructura y transporte urbanismo y también desde luego distribución redistribución

de la riqueza por lo tanto nosotros vamos a votar a favor de esta enmienda de transacción a la que han llegado

del partido socialista a mí me ha parecido entender que ha hecho una crítica a un modelo desequilibrado de nuestra comunidad autónoma

énfasis en el papel que juegan ahí las capitales algún otro grupo también ha hablado de esta cuestión nosotros estamos de acuerdo y ya hilado esto

tiene que hacerse no solo desde los municipios de esta comarca

desde las instituciones supra municipales donde creo que ustedes

el gobierno vasco y el gobierno de españa y también en este caso de la capital del territorio histórico donostia desde donde también se está impulsando

que parece que usted también ha criticado lo digo a modo de reflexión porque sí que me ha parecido una consideración importante nosotros votaremos a favor
de esta iniciativa y trabajaremos para que esa ponencia sí pueda llegar a buen puerto eskerrik asko hernández jauna erantzunen txandan

sí gracias presidenta no tenía intención de intervenir en esta segunda parte debate pero si se me permite voy a aprovechar primero para saludar a los alcaldes de los

y para hacer alguna

comunicación en respuesta a lo que se ha

que efectivamente yo creo que la pregunta no es por qué no otras comarcas sino por qué esta y el hecho es que si se ha solicitado

de todos los grupos parlamentarios es porque lo necesita y porque lo necesita porque hay datos hay indicadores solo hace falta buscarlos no

es analizar esos datos el núcleo de la intervención del grupo socialista en esta iniciativa ha sido la de contar a

que le puedo dar ahora por ejemplo ya sabe usted que los efectos de la crisis del año dos mil ocho al dos mil catorce

a constatar empezaron a notarse más tarde en dos mil nueve y eso también retrasó el periodo de recuperación

ha ido mejorando hasta que ha llegado la pandemia hay datos que son clarificadores por ejemplo durante estos años dos mil nueve dos mil diecisiete han desaparecido cincuenta y siete empresas industriales

trabajadoras asalariadas esto supone el nueve coma treinta y nueve por ciento del tejido

lo que supone la destrucción de empleo ha supuesto la desaparición de ciento veinte empresas la covid desde diciembre de dos mil diecinueve una reducción de más del veintidós por ciento en un periodo de quince meses es decir una quinta parte de nuestras empresas industriales esto

hay datos luego si usted se va a los datos estadísticos en relación con la demografía también verá

en función de lo que los grupos parlamentarios creamos oportuno pero lo cierto es que la pregunta es

y esto lo ha decidido todo el arco parlamentario al señor hernández

de la casualidad ni de un capricho es que esto me gusta más que aquello porque en fin

están clarísimamente expuestos en el apartado tercero que es

una ponencia en esa ponencia la agencia de desarrollo local concretamente debabarrena con el resto de actores que pueden ser empresas

los planes el plan que sea para salir de esta situación yo he puesto sobre la mesa

la polarización en las capitales perjudica a las comarcas que están en situación como la nuestra

puede ser una oportunidad y de eso se trata de buscar también oportunidades porque el hecho de que estemos en un sitio que es coocéntrico digamos con equidistancia a las tres capitales como bien decía la representante del pnv la señora berasaluze

objeto de problemas pero también objeto de oportunidad y ahora solo depende de nosotros

y que de donde hay problemas saquemos

necesidad virtud saquemos oportunidades y consigamos mejorar sustancialmente la situación de esta comarca de nuestra comarca de debabarrena que es en definitiva para lo que

interpretaciones sesgadas del marco competencial vasco se están produciendo un reposicionamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en euskadi

sobre la base de una interpretación parcial de la ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad

que el artículo diecisiete del estatuto de autonomía atribuye a las administraciones de euskadi en materias tales como la seguridad ciudadana el tráfico o las emergencias reposicionamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado entrando en determinados nichos

behar según los últimos datos en araba gipuzkoa y bizkaia hay dos mil novecientos diecisiete policías nacionales y guardias civiles y nadie es capaz

por qué la presencia de fuerzas de seguridad del estado es absolutamente innecesaria y arbitraria es además rechazada por una gran

sociedad vasca que además vía cupo se ve obligada a pagar la factura hoy en día bajo qué título

qué servicio prestan a la ciudadanía para qué

yo tengo mi propia teoría de por qué permanecen en este país después de una situación de conflicto político

no porque aportan ninguna solución en términos de seguridad sino para

un relato concreto un relato de pasado el mantenimiento de los controles de carretera por parte de las fuerzas de seguridad del estado es una perversión de sus competencias

pero además de ser una perversión de las competencias es preceptiva la comunicación al departamento de estos controles algo que no se está cumpliendo continuamente se nos están ocultando datos

ocultando cuántos controles dónde y por qué he preguntado año

y este sería el gráfico que he conseguido con los datos que me han ofrecido y también tengo que apuntar con los que no me han ofrecido en el año dos mil quince

en el año dos mil dieciséis mil novecientos veintiocho un descenso importante en el dos mil diecisiete mil setecientos cincuenta y uno bajan otra vez a mil seiscientos cincuenta en bi mila hemezortzi

que caen hasta dieciocho en el primer semestre

pido los datos restantes es decir del año y medio que hay entre medio y se me dan solamente los datos del segundo semestre

controles de carretera un error

solicité de nuevo información con respecto a los otros dos semestres y me dicen desde el departamento que no me lo van a dar que ya me han respondido no es así solicito a la mesa amparo y nuevamente se me vuelven a

porque efectivamente conseguir datos del departamento muchas veces es una verdadera pelea harira bi mila hemezortzitik

son fiables estos datos estos números no son profundamente inexactos e incorrectos estos datos parten principalmente de dos conceptos uno los controles que el ministerio de interior comunica al departamento y otros los que la propia ertzaintza detecta

que son aproximadamente la mitad y habría que añadir como digo los controles que el departamento no detecta no controla el señor erkoreka me respondía

decisiones en dos mil tres el pnv firmó con nosotros una solicitud de retirada de la guardia civil y la policía nacional bien

a su estricto ámbito competencial hoy vuelven con esta posición que será la que salga votada no cambian la reclamación pero sí que interpreto que cambian las circunstancias entonces

gobernaba el pp el psoe no tenía ninguna responsabilidad sobre lo que estaba decidiendo no estaba en sus manos llevarlo a la práctica era en cierta manera un brindis al sol pero hoy sí que creo que con esta decisión

la obligación de dar pasos y la capacidad para cumplirla esta iniciativa va a estar directamente hoy sobre la mesa del señor itxaso

y nos parece bien no nos opondremos es más seremos exigentes para verificar que se cumpla decía que quedaban

con esta reclamación que hoy finalmente se va a aprobar de adecuación a su estricto ámbito competencial es decir aduanas puertos aeropuertos y poco más

la casi totalidad de cuarteles y comisarías en este país deberían cerrarse y por supuesto

en nuestras carreteras y no está mal y tal vez a ustedes señores y señoras del pnv y del pse les parezca suficiente pero a nosotros no

la retirada el repliegue total de las fuerzas de seguridad del estado hasta que se cierre el último cuartel hasta que se cierre la última comisaría en este pueblo hasta que el último efectivo de la guardia civil y la policía nacional se vaya de este país

para que vean que no se ocultan datos les voy a hacer el balance de actuaciones en euskadi de la guardia civil y la policía nacional solamente del pasado año dos mil veinte

a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado debemos la liberación de treinta y seis personas la mayoría mujeres y niñas víctimas de redes de trata de seres humanos la desarticulación de dos células yihadistas y veintiuno bandas de delincuencia organizadas la guardia civil detuvo a la etarra miren itxaso zaldua

algo que seguro no gustó al grupo proponente de la iniciativa que aquí discutimos

además sus investigaciones sobre tráfico ilícito de armas hicieron posible la incautación de cuarenta y nueve armas cortas

en sus funciones de resguardo fiscal del estado en el recinto aduanero de aeropuertos la guardia civil levantó cuatrocientos cuatro actas de aprehensión

más de quinientos kilos de productos cárnicos y lácteos setenta y ocho kilos de productos farmacéuticos y cosméticos una tonelada de semillas plantas y productos vegetales decenas de objetos figuras y partes animales y más de mil quinientos artículos de ropa calzado marroquinería

en su labor de vigilancia de costas y salvamento marítimo la guardia civil durante el año pasado práctico cuatrocientos setenta y cuatro inspecciones de embarcaciones recreativas y profesionales en las que se detectaron un total de ciento cuarenta y cuatro irregularidades sobre el uso indebido de embarcaciones

y por si no fuera suficiente la guardia civil veló por la seguridad en treinta y seis pruebas deportivas remolcó veinticinco embarcaciones

en nueve búsquedas de desaparecidos en el mar por todo lo anterior alguien puede llegar a pensar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado suponen una amenaza para la seguridad pública tal y como el consejero de seguridad se ha atrevido a plasmar en el plan general de seguridad pública de euskadi dos mil veinte dos mil veinticinco que osadía por cierto es lógico que la guardia civil realice controles antidroga en carreteras sin avisar

amparados por supuesto en la lucha contra el narcotráfico que sí es competencia de la guardia civil sé que el pnv se va a resistir a reconocer algo bueno en el servicio que el instituto armado presta y ha prestado en euskadi

pero no importa porque los datos que acabo de repasar además de forma muy somera hablan por sí solos y solo hablan de lo hecho en un año de pandemia en el año dos mil veinte

para felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado por su trabajo en el país vasco y en el resto de españa garante de los derechos y libertades de las personas

no me cabe la menor duda de que eh bildu sortu al presentar esta iniciativa les mueve

señores sí los queremos y sí los necesitamos la guardia civil y policía nacional desempeñaron un papel fundamental en la lucha antiterrorista desde aquí décimos al gobierno que vox lo que quiere es apoyar la colaboración y coordinación entre cuerpos y fuerzas de seguridad del estado ertzaintza y policía municipal

que tiene la fecha en mayo a principios de mayo y es importante retener la fecha

algunos hechos de bastante interés que también relataré posteriormente hasta ahora

por controles decía que los controles de la guardia civil suponen una demostración de violencia y una persecución hacia la ciudadanía en esta pnl ciertamente se habían cuidado mucho más los términos y hablaba de

sin comunicación pedía que se cumpliera la ley que se haga un informe de invasión competencial que se recuperen competencias por parte de las policías vascas que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado se atengan a sus competencias

pensé que ese tono legalista autonomista y respetuoso con las funciones de la policía

ciertamente estábamos ante un trampantojo porque lo que ha estado explicando aquí en su intervención dista mucho de ese tono

con prepotencia militarista que no los queremos en nuestras carreteras que no los necesitamos que la mayoría de la sociedad vasca rechaza esta policía que

asentar un relato sobre el pasado y después con ese fino estilo que le caracteriza a tenor de cómo expresa las cosas

ya nos ha terminado diciendo cuánta policía hacía falta que viene a ser y cuánta guardia civil que viene a ser un diez por ciento de la actual aunque en su pretensión está que no haya

sabemos cuál es su posición política ciertamente ha cambiado muy poco está excesivamente

en esta repetición de este derbi esto es como los partidos de clásico alavés

pues todos los años aparece tiene que aparecer y bueno

pero nos dan la oportunidad de hablar de competencias y de seguridad y me parece muy bien que hablemos de competencias y de seguridad mire la guardia civil

vigilancia de costas y fronteras vigilancia de puertos y aeropuertos resguardo fiscal del estado lucha contra el terrorismo en policía judicial

tratas de seres humanos pornografía infantil robos estafas secuestros la policía nacional tiene competencia en extranjería en tramitación de documentos

en falsedades documentales en tramitación de documentos de identidad pasaportes en verificación de identidades en policía judicial tiene también tareas en crimen organizado operaciones antidroga falsedad documental estafa

por las competencias y funciones que tienen la policía nacional y la guardia civil

en los despachos que tienen que hacer trabajos de investigación en los laboratorios

por lo tanto creo que las tareas que ejercen obviamente están adecuadas a las competencias que tiene establecidas no voy a decir cuáles han sido los resultados en todos estos campos en todo este tiempo

que son los datos que hace poco expresó el delegado del gobierno en el país vasco por lo tanto ya se han dado pero sí añadiré que además de todos estos resultados en la lucha contra el crimen

y en defensa de la seguridad de los ciudadanos en el tiempo de la pandemia también se ha trabajado de manera coordinada entre todas las fuerzas

de coordinación operativo y hay que decir que se han mantenido muchísimas

y me atrevería a decir porque se atreve a decirlo también el consejero que las relaciones están

bastante razonable bastante bueno con avances importantes que se significaron después de cuando usted

esta iniciativa porque efectivamente el dieciocho de junio hubo una junta de seguridad y en esa junta de seguridad la colaboración de la policía vasca con

la consejería de interior con el ministerio correspondiente hicieron un rosario de acuerdos muy interesantes

y que van desde compromisos en materia de violencia machista para la conexión

al acceso a la información por parte de la ertzaintza

a competencias concretas sobre el vuelo de drones tan eficaz también para la seguridad hubo acuerdos en materia de medio ambiente para el refuerzo de competencias y la coordinación con el resto de fuerzas hubo acuerdos

al plan estratégico es decir como se puede comprobar la junta de seguridad del dieciocho de junio fue una junta de seguridad productiva con unas relaciones

donde se avanzó mucho donde así se significó por las dos partes

toda la argumentación si se le puede llamar argumentación que yo diría

que usted ha hecho en su relato en su intervención yo afirmo que entre policías afirmo que entre policías hay buena comunicación

se ha dejado de trabajar en la comisión permanente de cooperación aunque no haya tenido tantas reuniones la junta de seguridad como probablemente

pero que ha habido esa coordinación que hay líneas de trabajo conjuntas para mejorar el servicio público de seguridad a la ciudadanía y que además se está trabajando en línea con las propuestas de la unión europea con los

es evidente por los datos que también se han colocado encima de la mesa y que recientemente

en euskadi explicó euskadi no está exenta de delincuencia no está exenta de acciones violentas de terroristas de contrabandistas del terrorismo internacional y por tanto parece que en euskadi en estos momentos la suma de policías es una suma que es positiva y que va en apoyo y ayuda a la seguridad ciudadana que por cierto la seguridad ciudadana uno de esos servicios públicos que la propia ciudadanía valora muy positivamente junto a otros servicios de los que muchas veces hablamos porque son más amables o porque tienen otro tipo de aportación a la ciudadanía pero

lo mismo que los derechos valen lo que valen sus garantías los derechos y sus garantías valen lo que vale también la seguridad y por tanto la seguridad es

y de los servicios públicos esenciales que se facilitan a la ciudadanía

lo que usted plantea en su iniciativa no tiene demasiado sentido es cierto que

desde hace ya algunos años que es clara y que la reafirmamos con la enmienda de totalidad que hemos presentado es cierto que queremos que haya una buena colaboración entre las policías defendemos como no puede ser de otra forma porque además estamos implicados

la gobernanza y por tanto el desarrollo de las competencias que esa gobernanza implica estamos absolutamente identificados y trabajando

de otra forma y por supuesto que queremos que haya respeto competencial y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que la policía

más explícitos en orden a sus competencias tengan sus efectivos y por supuesto que esto determinándose por la colaboración por la cooperación de ambos gobiernos por lo que se resuelva en la junta de seguridad y en esas relaciones

y desde luego como bien a la sociedad vasca y al conjunto de la humanidad no lo dejaremos en sus manos eskerrik asko

gehiagotan ekarri baidute gai hau legebiltzarrera lo cierto es que si hoy debatimos de nuevo acerca de la invasión competencial que por parte de policía nacional y guardia civil se vienen realizando frente

es porque constatamos una realidad que no es otra que cierta resistencia por parte de ambos cuerpos

y remitirse a sus estrictas tareas encomendadas por el marco legal vigente

sigue pendiente de ordenar la labor de la policía nacional y la guardia civil en la comunidad autónoma vasca y lamentablemente

esperemos que no policía nacional y guardia civil pese a la desaparición de eta no han reducido su papel

hoy en el aniversario de la conformación del primer gobierno vasco en mil novecientos treinta y seis hace ochenta y cinco años estamos nuevamente exigiendo que se cumpla la ley en este caso que se cumpla el estatuto de gernika aprobado hace cuarenta y dos años y que se respete

eskatzen ari gara berriro como les decía desde el fin de eta la policía nacional y la guardia civil han hecho un ejercicio de reubicación de sus labores en euskadi

que justifican en base a ciertas interpretaciones sesgadas en nuestra opinión del marco competencial vasco

fuerzas y cuerpos de seguridad en euskadi tal y como señala el proponente esta afirmación queda recogida en el plan general de seguridad pública de euskadi dos mil veinte dos mil veinticinco

en el que este tipo de cuestiones debe resolverse es la junta de seguridad del país vasco las eventuales transgresiones competenciales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado

articulados respetando el reparto competencial estableciendo en el artículo diecisiete del estatuto de autonomía del país vasco y los acuerdos de delimitación de servicios debiéndose ajustar las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado a su estricto

en este sentido debemos apuntar que se ha producido una cierta normalización en este aspecto entre las relaciones entre nuestro gobierno y el ministerio de interior

del pasado mes de junio ha sido

por los acuerdos alcanzados y porque no podemos olvidar que este órgano no se reunía desde el año dos mil diecisiete demasiado tiempo sin reunirse la junta

que esté marcada por el trabajo conjunto el diálogo y los acuerdos en una materia tan importante como es la seguridad pública

tras la reunión de la junta de seguridad interconexión de los programas

de las mujeres víctimas de violencia machista para reforzar su protección y facilitar su movilidad segura acceso de la ertzaintza a la información y expedientes europol e interpol

para reforzar la cooperación en los ámbitos internacionales los ámbitos de cibercriminalidad y medio ambiente este es y debe ser el camino que en nuestra opinión debemos seguir sin renunciar ni a una sola de las competencias que le corresponden a la ertzaintza como policía integral

y el respeto será posible poner fin a la invasión competencial

compartimos con el proponente que esta invasión competencial debe cesar

en el marco de la junta de seguridad y además de rechazar hay que arreglar hay que solucionar hay que usar los canales adecuados que ahora parecen de nuevo abiertos para solucionar los problemas

por esa misma razón no contemplamos la elaboración del informe diagnóstico que se propone

insta al gobierno de españa a la adecuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado al estricto ámbito de sus competencias gure asmoa da

nuevamente estamos pidiendo compromiso compromiso con la ertzaintza como policía integral

gracias presidenta de nuevo lehendakari consejero señorías

nada nuevo con esta iniciativa de bildu nada nuevo el otro día hablaba de las soluciones de la utilidad de las iniciativas pues nada nuevo señor arzuaga en relación con su posición y con su

no podía faltar desde luego en esta legislatura también la expresión del que se vayan del alde hemendik ahora en versión

de su grupo de la izquierda abertzale en este parlamento conocido el obsesivo odio y la animadversión que existe en su grupo ahora disfrazada también

del señor arzuaga ya las conocemos mire

llevan aquí mucho tiempo ya estaban aquí cuando se creó la ertzaintza y por eso

hacían sus funciones y con acierto se acordó el artículo diecisiete del estatuto de autonomía del país vasco y nosotros entendemos que básicamente

y no ha habido grandes elementos que digan lo contrario en relación

se cumple se cumple el artículo diecisiete del estatuto de autonomía

porque estaban y se mantienen y se mantendrán

las competencias que tienen las leyes lo dicen las competencias constitucionales

diecisiete del estatuto de autonomía sino de otros estatutos que regulan los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado

que planteaba una iniciativa que se aprobó en este parlamento de condena de los actos violentos y a la vez de apoyo

hoy se ve que le ve valor y que le ve soluciones a esta iniciativa suya que no deja como siempre de tratar de

calificativos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que

de quien hace un buen trabajo un magnífico trabajo y lo ha hecho en nuestra sociedad puede haber alguna cuestión discutible

pasa siempre existen ámbitos de diálogo y de colaboración

de diverso signo locales municipales estatales forales

pero hay ámbitos de acuerdo y ámbitos que funcionan yo suscribo

la intervención que ha hecho también explicativa de la situación actual el señor

hay muchos vascos que necesitamos a la guardia civil y a la policía nacional y que les queremos

que sabe que hay muchos vascos que les reconocemos que les queremos y que los necesitamos entre nosotros porque mire

ahora sale como término mantra el tema de la invasión competencial

significado de invasión que tiene la real academia tiene diferentes acepciones irrumpir no irrumpir no hay una serie de protocolos de leyes el artículo diecisiete

las leyes de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que permiten y que establecen sus visiones aquí no irrumpir pues no irrumpen entrar por la fuerza tampoco ocupar

porque tienen esas leyes de las que hablamos a veces

de actuación entrar y propagarse en un lugar o un medio determinado entrar injustificadamente en funciones ajenas no no no en funciones propias funciones propias

no la hay en los términos que hay porque hay sometimiento y hay leyes que funcionan y lo que sí que ha habido y lo que sí que entendemos es otra cosa ha habido colaboración y lo vemos

y qué es lo que tiene que haber y lo que nosotros desde luego entendemos que hay básicamente básicamente en lo que es la seguridad de este país

pero también donde la policía nacional y la guardia civil tienen sus importantes funciones

y desde luego además de la ley dos barra ochenta y seis de fuerzas y cuerpos de seguridad donde figuran los cometidos de la guardia civil la policía nacional está el estatuto de autonomía claro ha dicho el artículo diecisiete pues también hay que decir hay que ver lo que dice el estatuto

en forma de que se termine en este estatuto el régimen de la policía autónoma para la protección de personas el mantenimiento del orden público dentro del territorio

policiales de carácter extracomunitario y supracomunitario

salida en territorio nacional de españoles y extranjeros régimen general de extranjería

resguardo fiscal del estado contrabando fraude fiscal del estado o sea que

porque si no no lo estaríamos del todo y está claro que bien también habla de la coordinación y ya se nos ha hablado de eso y otros casos en los que

puedan intervenir de otras maneras más excepcionales y previstas y reguladas o sea que en ese sentido

la cosa está bien la cosa ha funcionado satisfactoriamente

y lo ha hecho en ámbitos claros

si hay controles u otras actuaciones es porque tienen ámbito de actuación que permiten hacer esos controles es decir claros ámbitos de actuación

drogas crimen organizado tráfico de personas crímenes ecológicos evasión de capitales

traficantes varios contrabando policía judicial es que hay mucho ámbito de actuación los jueces pueden encargar misiones a estos cuerpos policiales

hemos hablado de cuestiones supracomunitarias extracomunitarias que afectan a nuestra vida diaria

o sea que en ese sentido yo creo que hay que enfocar

por la vía de la colaboración hablando de colaboración es que

el grado de estrecha colaboración y para el bien de todos que existe entre la las policías locales y los cuerpos de seguridad del estado es que

a nosotros por lo menos nos lo dicen y lo ponen de manifiesto recientemente hemos visto actuaciones conjuntas en relación con el tráfico de drogas pues bueno

lo que es el día a día para beneficio de esta sociedad y deshacer esa colaboración que existe que existe de hecho

en perjuicio de nuestra seguridad y nosotros queremos estar seguros y nosotros para estar seguros necesitamos

y los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en cumplimiento de la ley suya que la regula y en cumplimiento del artículo diecisiete del estatuto de autonomía que

que se vayan y no les queremos y que se retiren

que plantea el señor arzuaga siempre que el pnv también plantea de vez en cuando y que

que no se cumplan las leyes hacer un discurso político del que se vayan

para consumo interno para satisfacción de la parroquia

es decir radical reflejar en una iniciativa parlamentaria cuestiones que nada tienen que ver con la realidad y con las proclamas varias y yo lo que sí que quiero hacer desde luego es aprovechando esta oportunidad que me da

a la guardia civil y a la policía nacional por su trabajo por su trabajo en esta tierra por su trabajo heroico encomiable en relación con la defensa de la vida de las personas con la desarticulación del terrorismo y también con otros trabajos que tienen que ver

miles de vascos han sido salvados en situaciones críticas por la guardia civil aquí en el país vasco pero también

los jóvenes y las mujeres los hombres que deben su vida a la guardia civil muchos muchísimos y por no hablar de

que deben su vida a la guardia civil y que estamos aquí sentados y que no somos precisamente

presidenta buenas tardes a todos la iniciativa que eh bildu registró

ya se contempló en la junta de seguridad del país vasco pues fue objeto de esta junta aclarar las competencias y delimitar los ámbitos de actuación entre la guardia civil y la ertzaintza en euskadi de hecho

va encaminada a continuar con las reuniones de esta junta de seguridad y a seguir esclareciendo las diferencias competenciales y el marco de actuación del seprona

esperamos que en un futuro el representante del pnv y de los partidos que sostienen al gobierno

hay más fechas para esta junta así como nos den información transparente

dando pues de lo que se trata entre otras cosas es de saber si la ertzaintza va a poder tener capacidad y personal y los medios para investigar y perseguir los delitos ambientales en euskadi de la misma manera en los que lo hace el seprona y es que en estos momentos la unidad verde de la ertzaintza

y desde nuestro grupo parlamentario creemos que existe una completa insuficiencia de medios para investigar este tipo de delitos además también existe una descoordinación que ya el propio ararteko ha denunciado a pesar de

y falta de claridad en el ámbito competencial entre la ertzaintza y el seprona

de ríos de montes pertenecientes a administraciones como al gobierno vasco diputaciones

en un río y contaminara este río con mortalidad de peces en un espacio protegido y a pesar de que se han trabajado protocolos para ir saliendo del paso no está claro

en qué ámbito de administración estaría para muestra un botón se le ha asignado a ura muestras de los peces muertos cuando en realidad esto les corresponde a los agentes de caza y pesca de la diputación de hecho

la existencia de disfunciones en la ertzaintza ya que gracias a la carga de trabajo

saturó a las diez personas que están en esta unidad y tuvieron que archivarse muchos delitos que quedan impunes y esta impunidad

porque saben que tienen más recursos para perseguir este tipo de infracciones lo hemos visto con las investigaciones de los vertidos de amoniaco en la incineradora de zubieta en los vertidos del río zadorra o

en la desarticulación de una organización que exportaba ilegalmente a residuos

estas situaciones dejan patente que es absolutamente necesario replantear el sistema vasco de inspección y vigilancia y dotarlo de los recursos humanos y técnicos necesarios para ello

en la pasada legislatura desde elkarrekin podemos mediante pregunta oral insistimos en hacer efectiva una pnl aprobada en este mismo parlamento en dos mil quince que

cuentas instaba a desarrollar la estructura los recursos y la formación

y las administraciones forales y locales en su intervención la señora consejera defendió el gran trabajo de esta unidad

las múltiples acciones formativas de ella es decir la gran mayoría de las tareas que realiza esta unidad eran de formación a terceros

sobre la pregunta oral que se realizó la pasada legislatura

aprobada y no desarrollada ahora como entonces nos parece que la respuesta no fue adecuada y que en dos mil veintiuno seguimos con los mismos problemas que en dos mil quince y en dos mil diecisiete

no es de interés de las administraciones parece que hacen oídos sordos a las peticiones de la fiscalía el ararteko e incluso este mismo parlamento desde elkarrekin podemos hemos presentado muchas iniciativas en este sentido la última

en las que volvimos a insistir y hemos pedido el refuerzo del personal con competencias en inspección vigilancia ambiental y mejorar la coordinación existente entre las administraciones por todo ello

sino en crear una organización de inspección y vigilancia ambiental de primer nivel para investigar y perseguir los múltiples delitos ambientales que se dan en euskadi es hora de empezar a dotar de más recursos humanos y técnicos a la ertzaintza

inspector de la administración vasca entonces euskadi dejará de ser el paraíso de la impunidad que es hoy con respecto a los delitos ambientales

porque todo ha estado bien porque todo ha estado fantástico y soy yo sufro de animadversión y tal vez sea porque sé lo que ha pasado y usted sale aquí a dar lecciones de pretendida superioridad ética y no sé si hoy querrá expresarse en recuerdo y en memoria de un cartero

de veintidós años josé antonio cardosa morales y no sé si usted que lo condena todo también será capaz de condenar a un ministro de interior a un ministro de interior de su partido a un ministro de interior que se cobija bajo las siglas psoe

a simpatizantes de herri batasuna por conducto de la guardia civil de intxaurrondo y lo sabíamos pero ahora tenemos la constatación porque así lo ha dicho

porque les señala directamente y le interpelo para que nos dé una explicación porque esa pretendida superioridad ética

históricos y porque euskal herria merece una explicación y merece toda la verdad el señor barrio nos dice que

precisamente el doce de octubre no dudo que se les dará

les tratarán como héroes como vencedores precisamente en contraste con sus víctimas

las olvidadas las que se encuentran con una pared con un muro infranqueable para intentar conseguir verdad y justicia

a perpetradores de vulneraciones gravísimas de derechos humanos esos mensajes de apología y enaltecimiento a los servicios prestados porque lo han hecho

esos mensajes no humillan a las víctimas esos mensajes de enaltecimiento y apología

un apoyo son una aportación a la convivencia en este país se harán eco del dolor de estas víctimas en esos actos hoy hablamos de controles de carretera y de sus víctimas mortales habrá el doce de octubre un recuerdo

hacia javier batarrita manuel andueza josé díaz

josé emilio fernández felipe carro diego alfaro francisco caballero mikel arregi para la pareja maría ángeles barandiaran o victoriano aguiriano hemen gamarran hildakoak

hablando de hipocresía señor arzuaga entiendo que como también ha hablado de carteros

que fue asesinado por eta suponemos que bildu también tendrá un sentido recuerdo para él espero que sí que así sea tengo que reconocer que es enorme el papel que la guardia civil la policía nacional han jugado

y a españa de la amenaza real de eta que hemos tenido y hemos sufrido tengan por seguro que nos sentimos muy muy seguros y protegidos cuando los vemos en carreteras y montes

lo que tenemos claro es que ustedes ven mal homenajear a la guardia civil les parece un despropósito ahora está muy bien agasajar y homenajear a asesinos en serie como parot eso sí que lo ven bien dicho esto en vísperas del día doce de octubre día de la hispanidad desde vox trasladamos nuestro agradecimiento y gratitud a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado

presidenta señorías primero voy a dar alguna explicación en relación con lo que se sustancia aquí

con lo que se sustancia aquí en realidad ni tan siquiera la enmienda que hemos presentado nosotros tiene demasiada importancia

acordémonos de en qué fecha se presentó esto y qué ocurrió después

de junio y posteriormente la valoración que el propio

realmente presentan la enmienda a la iniciativa suya mire cosas que dijo el señor erkoreka que usted dice que no tiene información pero yo las saco de los periódicos

dice si hubo reticencias con las policías autonómicas no tiene sentido con este pacto seremos más eficaces le preguntan ha dado un salto cualitativo la relación bilateral con el estado en materia de seguridad con los acuerdos suscritos y dice el salto cualitativo procede del hecho de que tras cuatro años sin reunirnos la junta de seguridad por fin hemos conseguido que lo haga

más adelante le preguntan el repliegue de las fuerzas de seguridad del estado en euskadi ha quedado fuera del orden del día y contesta no lo hemos abordado lo primero es delimitar competencias y una vez se haga podremos hablar de efectivos y números lo que nos preocupaba más establecer mecanismos de cooperación bueno esto es en el estadio en el que estamos ahora y por lo tanto su iniciativa es de las antípodas

y que habrá roces entre todas las policías del mundo no de euskadi no de euskadi con españa en euskadi con las policías municipales del mundo

ya sabemos que los egos los celos entre policías son habituales y a veces hay

o lo que fuere pero por supuesto siempre más allá de esos roces en favor de la seguridad de la ciudadanía por el conjunto de las policías

mi supuesta superioridad ética yo creo que es un complejo de usted no es algo que yo exhiba es

y usted sabrá por qué y probablemente con lo que diga ahora le ayudaré a que sepa el por qué usted dice si condenamos que haya habido

un cargo político si eso se demuestra

condeno todas las violencias hayan sido ejercidas por personas que estaban en un gobierno o en distintos gobiernos o hayan sido por funcionarios o haya sido por quien haya sido

condeno la violencia de eta usted no quizás ahí empieza la superioridad moral

sino porque usted tiene ese complejo porque yo sí condeno todas las violencias y que todos los que hayan ejercido la violencia

y por eso probablemente ve usted superioridad política porque yo estoy dispuesto a que todas las policías sigan trabajando para que se esclarezcan los trescientos asesinatos de eta

y quizás usted desde su inferioridad ética o desde donde quiera pudiera colaborar en esto porque estoy seguro que sabe mucho más que yo y que puede ayudar mucho más que yo por lo tanto si quiere

tendremos cuerpo a cuerpo si quiere que hablemos de superioridad ética hablamos de superioridad ética y así están las cosas

konpontzeko edo konponbide bat aurkitzeko señor barrio me ha parecido entenderle que ustedes están satisfechos con la situación actual

y evidentemente pues podemos estar hasta cierto punto de acuerdo con ustedes de unos meses a esta parte pero

afirmación evidentemente no compartimos el diagnóstico

ha habido problemas hay problemas pueden solucionarse los problemas y deben de solucionarse

si no pasa nada de qué me están hablando ustedes si como estamos estamos de maravilla

no podemos estar para nada de acuerdo ustedes estaban satisfechos y están satisfechos con el statu quo que teníamos por ejemplo cuando sus gobiernos negaban la

cuando se negaban a convocar la junta de seguridad

concreto afortunadamente creo que quedarán atrás

esas prácticas de claro desgaste de nuestra policía esperemos que pertenezcan al pasado y que queden en el pasado bukatzeko

gracias señora presidenta señor atutxa estamos satisfechos sí sí lo he explicado muy bien

de mi intervención estamos satisfechos y lo estamos desde hace mucho tiempo con la actuación de la guardia civil y de la policía nacional

por su trayectoria y por sus actuaciones estamos satisfechos los gobiernos

hacen cosas que se pueden discutir y lo hacemos y lo discutimos lo discutimos en este parlamento se discuten y se pueden discutir en el congreso de los diputados en el senado se pueda hacer control al gobierno incluso si hay cosas que entre gobiernos no funcionan pues se puede acudir a los tribunales para determinados órganos no funciona lo pueden

de la administración el funcionamiento normal y ordinario de las instituciones pero con lo que sí que le aseguro que estamos satisfechos y muy satisfechos

de la guardia civil y de la policía nacional en nuestra tierra y en el país vasco porque entre otras cosas muchos de nosotros o muchas personas en este país les deben la vida señor arzuaga doce de octubre allí estaremos allí estaremos si nos invitan como lo suelen hacer

con ellos como siempre lo hemos hecho es decir y agradeciéndoles y pasando

con ellos y desde luego animarles a que sigan su labor y desde luego

a la policía nacional les debemos mucho a algunos y también desde luego les reconocemos sus esfuerzos su trabajo y sus sacrificios

ciento cuarenta y seis policías nacionales siempre merecerán

habla el otro día decía que perdía otra vez otro tren en relación con algunas cuestiones básicas de nuestra convivencia

se olvida siempre de tantas cosas se olvida que quedan en evidencia es decir el señor arzuaga es

y se le nota tanto de lo que se olvida de lo que se olvida que luego lo que diga

no tiene ningún sentido es decir usted se olvida de tantas cosas tiene tantas asignaturas pendientes tiene tantas carencias

trenes en relación con la condena de la violencia y el apoyo a la policía autónoma y hoy se queda en evidencia en relación con sus olvidos nosotros creemos

y condenamos todo todo lo que se haga contra las leyes contra la justicia toda la violencia desde luego que se haga de esa manera

esa asignatura pendiente siempre condenaremos toda violencia siempre lo hacemos y siempre lo haremos y siempre lo hemos hecho

he visto la enmienda del partido nacionalista y el partido socialista no podemos apoyarla porque señor el segundo punto el parlamento vasco insta al gobierno de españa a la adecuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado al estricto ámbito de sus competencias hay un ámbito de desconfianza que nosotros no compartimos

y parece que está satisfecho el gobierno vasco y el gobierno de españa en este momento de esas situaciones pues aquí

hay un ámbito de desconfianza que nosotros no compartimos y que nos impide votar a favor muchas gracias

la verdad es que lamento que sea tan tarde y reconozco que he tenido múltiples sugerencias por parte de prácticamente todos los grupos para aplazar la cuestión sí pero

especialmente importante siempre tiene que ser buena hora para hablar de educación y

la necesidad de poner gratis la educación infantil ese es el tema

proponer aquí una iniciativa esta cuestión que la educación infantil sea gratis es un avance que poco a poco se va abriendo paso en la sociedad el nueve de noviembre pasado tuvimos una comparecencia

y el catorce de diciembre se celebró un debate en la misma comisión en la que ya defendimos con toda claridad la gratuidad de la educación infantil

con independencia de los ingresos familiares y no como una medida excepcional durante la pandemia sino como una medida permanente esta es nuestra propuesta

en enero de este mismo año en la tramitación de los presupuestos se incluyeron enmiendas nuestras a los presupuestos vascos por valor de seis millónes de euros para este fin que como todas las demás fueron rechazadas de plano por los grupos del partido nacionalista y partido socialista

sin ninguna contraprestación el ocho de abril de este mismo año y con ocasión de la visita a euskadi de nuestro europarlamentarios luis garicano ya anunciamos a la prensa el registro de esta iniciativa que finalmente hoy debatimos

es una de las banderas que hemos defendido en diferentes comunidades autónomas y que ya se ha aplicado en sitios como andalucía donde fue aprobada

también se ha puesto en marcha y también lo hemos propuesto en navarra actualmente como

hay guarderías públicas y privadas susceptibles de recibir subvenciones

pertenecen al llamado consorcio haurreskolak del gobierno vasco y algunas más de titularidad municipal las familias están pagando una cuota que es diferente en función de los ingresos los ingresos de la familia y que es gratuita en dos casos muy concretos

nuestra propuesta es muy sencilla y muy clara implantar la gratuidad total para la educación infantil de cero a seis años

haurreskolak pero que solo es una posibilidad entre otras que se podrían considerar el cheque haurreskolak

el coste que les supone la matrícula de la educación infantil como una retribución más para fomentar la conciliación y luego este coste

como digo no es más que una posible fórmula no es que sea esta la única y estamos abiertos a considerar cualquier otra pero lo importante es el objetivo

la gratuidad de la educación infantil y creo que el objetivo espero que más o menos lo compartamos porque creo que tenemos

porque es tarde la primera o el primero porque creemos que se puede hacer con muy poco dinero o

pero la gerencia de haurreskolak reconoció en esa comisión de la que hemos hablado antes

por tanto lo que sí que parece necesario es hacer una reestructuración de las dimensiones de la red

y hay que hacer una adecuación a la demanda real que permitiría acometer la gratuidad

de su propio departamento de educación este curso ha habido un cinco coma ocho por ciento menos de matriculaciones

en la educación de tres a cinco años por otra parte será por dinero el gobierno vasco

que dotaba de veinticuatro coma cinco millónes de subvención a doscientos setenta y seis centros que ofrecían educación de cero a tres años

actualmente en la estructura de ingresos del consorcio haurreskolak las familias pagan en concepto de tasas

más o menos lo que viene a ser alrededor del nueve por ciento de los ingresos del consorcio

y más si tenemos en cuenta la importancia que tiene este tema la importancia que tiene la educación infantil en la trayectoria

de los niños y en la repercusión en la vida de las familias no

y si lo que necesitan es sugerencias sobre de dónde sacar el dinero

ya se imaginan por dónde podemos ir la segunda razón

es por razones pedagógicas está ya creo que ampliamente demostrado

el efecto beneficioso que sobre la educación de los niños tiene la escolarización temprana mejoran sus habilidades sociales incrementan su capacidad de comunicación

aprenden a gestionar mejor las emociones adquieren hábitos saludables respecto a la higiene el orden la alimentación el sueño

es obvio que la gratuidad incentivará el uso de la guardería especialmente para las familias

que las hay y tercera razón por la que creemos que está cuestión es importante y merece la pena defenderla es por conciliación

las escuelas infantiles resultan imprescindibles especialmente para aquellas familias en las que los dos padres trabajan y permiten una adecuada conciliación

una alternativa sin duda es contratar que contraten a alguien que cuide de los niños en casa pero eso solo se lo pueden permitir las familias más acomodadas

otra alternativa es recurrir a los abuelos a los que ya estamos explotando en algunos casos de forma abusiva ellos también necesitan conciliar con su descanso y con su jubilación que han ganado pulso a pulso

porque es el único tramo de educación que no es totalmente gratuito

y no se entiende muy bien por qué el tramo de educación infantil está penalizado económicamente por todo ello

por razones pedagógicas de conciliación y de homogeneidad con el resto del sistema educativo le proponemos a esta cámara

o cualquier otra medida que lleve la gratuidad de la educación infantil y que pueda ser aplicada en todos los centros del consorcio y de todos aquellos otros centros que gozan de autorización y supervisión por parte del gobierno vasco y nada esperando

en la intervención que usted ha hecho podemos decir que compartimos gran parte de lo que usted ha dicho en cuanto a la pedagogía en cuanto a la importancia que tiene el ciclo cero tres y en cuanto a la importancia de conseguir para la cohesión social y la equidad de las familias la gratuidad de las haurreskolas podemos llegar a compartirlo lo que no compartimos es que de repente hagamos

quiero decir en este parlamento más de una vez se ha aprobado

una resolución que dice que las haurreskolas progresivamente tienen que avanzar hacia la gratuidad lo que pasa que falta definir por el gobierno lo antes posible

que de repente como el gobierno no cumple esa propuesta

para que las empresas paguen a los trabajadores y las trabajadoras las trabajadoras y los trabajadores pagan la haurreskola la haurreskola comunica a gobierno vasco y gobierno vasco con beneficios fiscales

que no tendríamos por qué hacer si el gobierno cumpliera las resoluciones que en este parlamento ya se han aprobado es más le quiero recordar a usted

que ustedes su grupo sus compañeros de grupo en la rioja alavesa apoyaron una propuesta similar que decía que el consorcio de haurreskolak tenía que ser totalmente gratuito por lo que le invito

de nuestra enmienda tampoco tengo mucho más

bien buenas tardes prometo hacerlo breve dadas las horas no bueno hoy nos toca hablar otra vez del consorcio haurreskolak lo hemos hablado como decía el señor gil en muchas ocasiones

una entidad pública que gestiona las escuelas infantiles públicas de cero a dos años con objetos muy concretos en ese consorcio ofrecer un servicio educativo integral

así como la atención social especialmente en el ámbito de la conciliación de la vida familiar y laboral quiero hacer mucho énfasis en este aspecto fundamental para el consorcio

aspecto este por cierto que se ha mostrado importantísimo durante toda la pandemia a pesar de que tal como nos contó la

esa misma situación de pandemia provocó también una bajada en las matrículas de haurreskolak probablemente porque la permanencia durante el confinamiento en el domicilio de ambos progenitores

dicha conciliación en cualquier caso es una entidad que contribuye al desarrollo físico intelectual afectivo y social de niñas y niños con objetivos muy concretos impulsa y favorece las condiciones adecuadas también para garantizar el uso del euskera como lengua de comunicación y aprendizaje

su lengua vehicular haurreskolak apuesta por la coeducación por el proceso de educar para la igualdad

de tal manera que niños y niñas tengan las mismas oportunidades en un proceso de desarrollo

y atiende a los distintos ámbitos de aprendizaje y desarrollo de niños y niñas conocimiento y progresivo control del cuerpo que adquieren a través de experiencias construcción de las relaciones entre niñas y niños y el medio a través de los distintos lenguajes

el cien por ciento de escolarización a partir de los dos años y atención

en edades inferiores como las que atiende haurreskolak como partido político los socialistas vascos tenemos como objetivo la cohesión del sistema educativo vasco y una de las medidas imprescindibles para lograr esto es la gratuidad progresiva

de cero a dos en el sistema público y un sistema de ayudas a las familias trabajadoras en aras de la concertación y de la igualdad de oportunidades y en ese sentido como recordaba el señor arrese se han dado pasos en el consorcio para la gratuidad

se consiguió la gratuidad de las matrículas para las familias con ingresos iguales

que es solo un primer paso el compromiso debe ser ir aumentando los niveles de renta hasta conseguir la gratuidad total de ese espacio educativo pero como en todo para que esos avances se consoliden y sean definitivos y no fruto de la improvisación

de marcha atrás en ese sentido los grupos socialista y nacionalista hemos alcanzado un acuerdo para una enmienda alternativa a la propuesta del partido popular y ciudadanos

al gobierno vasco a apostar por ese consorcio como una herramienta fundamental de conciliación me parece que esos son elementos

impulsando la oferta educativa del primer ciclo de educación infantil teniendo en cuenta la demanda real existente y cuidando la adecuación de los servicios que presta el consorcio a las necesidades de las familias y a seguir reforzando las medidas de conciliación laboral a través del sistema establecido

modulando en función de la renta de las familias y permitiendo su extensión a un número mayor de familias y en cuanto a la propuesta concreta que nos trae hoy

cómo llamarlo especialmente ese punto uno en el que insta al gobierno vasco a implantar medidas como el cheque haurreskolak a través del cual

farragoso en primer lugar como decía nos parece farragoso y complicado el procedimiento y en segundo lugar con esa propuesta que usted hace es verdad que ha dicho que puede ser una más

en qué lugar quedan esas familias que por desgracia no tienen trabajo no tienen empresa a la que dirigirse son familias monoparentales tienen empleos

de organizar y además sinceramente a mí esa expresión del cheque escolar

y lo hacía como alternativa a la financiación pública de la educación me parece sinceramente muy poco presentable

hay que tener en cuenta que en ese punto se trata de establecer medidas a aplicar para facilitar el coste de las matrículas del consorcio haurreskolak y no para de rondón establecer una financiación extraña también para el sector privado de guarderías

principal del partido popular ciudadanos con esta iniciativa por eso ya le anuncio que a pesar de los buenos deseos que usted ha manifestado en esta tribuna

y nosotros desde luego apoyaremos la enmienda que hemos presentado junto con el partido nacionalista vasco eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak zabala andrea zurea da hitza

o qué pero de la iniciativa que hoy nos ha traído a las explicaciones que nos ha dado

no cuadra muchas contradicciones a ver si consigo explicarlo yo un poco mejor

exposición de motivos coincidíamos en varios puntos con ustedes uno los efectos positivos de la educación de cero a tres años sobre el desarrollo infantil dos

de la frase donde decía que especialmente de aquellas en las que los dos padres trabajan

sea obligatorio que los dos trabajen y tres en la gratuidad de las

en esos tres puntos coincidíamos e incluso en la mención que realiza sobre la necesidad de ayudar a las familias que debido al covid diecinueve han visto perjudicada su situación económica y para ello en la comisión de educación del catorce de diciembre del dos mil veinte como ya se ha mencionado aquí aprobamos un texto transaccional con los votos a favor de

euskal sozialistak euzko abertzaleak y la abstención de su coalición que decía seguir reforzando las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral profundizando en el sistema a través del sistema establecido para bonificar la matrícula del consorcio haurreskolak

la situación excepcional de las familias cuyas condiciones económicas hayan variado sustancialmente como consecuencia de la pandemia del covid

y usted mismo en aquella comisión y en distintas ocasiones nos ha recordado

basándose en la reivindicación del principio de igualdad de oportunidades principio de igualdad de oportunidades pero todo lo anteriormente dicho creo que confronta

la proposición no de ley que hoy nos ha presentado pese a la afirmación que realiza

a la escolarización de todos los niños y niñas de cero a tres años sin gravar la economía familiar pero en su primer punto

dicen el parlamento vasco insta al gobierno vasco a implantar medidas como el cheque haurreskolak a través de las cuales las empresas abonan a sus empleados ese coste que luego se compensa con beneficios fiscales

analizando este punto quería hacer unas pequeñas reflexiones uno

de igualdad de oportunidad que usted ha reivindicado más de una vez e incluso diría que

qué pasa con los trabajadores de las administraciones públicas no tienen derecho a según ustedes este cheque mágico y le formulo estas preguntas porque en este punto solo se refiere a los y las empleadas de las empresas

por otro lado pide que estas retribuciones en especie para los trabajadores que tienen obligaciones tributarias tengan beneficios fiscales para las empresas usted cree que estas medidas aportan algo al fin de la gratuidad de las haurreskolak que ayuda a las familias que peor lo están pasando como usted nos dijo el catorce de diciembre del dos mil veinte en la comisión de educación esta medida es

las necesidades de las familias y segunda reflexión en este mismo punto me sorprendí al leer la palabra implantar señor gil cuántas veces le hemos oído a usted decir que las empresas privadas no somos quiénes para decir qué es lo que tienen que hacer

vuelvo a decir que me parece que es una proposición llena de contradicciones nuestro compromiso con las haurreskolas está claro queremos seguir consolidando el presupuesto que año a año destina el departamento de educación dos queremos seguir ayudando a las familias mediante el sistema de bonificación y cuotas

sistema flexible que vaya adaptándose a las necesidades del momento y que permita que las familias con menores recursos

con plenas garantías tres queremos que la enseñanza que reciben nuestros niños y niñas

que la escolarización temprana acarrea para los y las menores pero también para padres y madres a la hora de conciliar la vida

eskerrik asko por favor sea breve y yo añadiría que clara que eso me recuerda a una serie de micro relatos que venían encuadernados en mi trabajo en la biblioteca por favor sea breve

objetivo de elkarrekin podemos izquierda unida para el cuidado de niños y niñas de cero a tres años

y todo lo demás son parches por eso la propuesta que hace

no nos parece una herramienta adecuada porque sigue estableciendo una diferencia en el acceso al derecho al cuidado en el acceso a la educación pública de la infancia

no es justo reconocer derechos en base a si somos unidades de trabajo productivas eso responde a una lógica exclusivamente capitalista y patriarcal los derechos fundamentales son los derechos a los que se tiene acceso

y no solo en base a su empleabilidad o a su situación regular administrativa esta iniciativa deja al margen el derecho a la educación

cuyos progenitores no cuenten con uno de esos dos requisitos además

por qué no se centran en un modelo en base a la renta que es lo que actualmente se conoce como cheque haurreskolak en otras partes en lugar están planteando una herramienta basada en incentivos o deducciones a las empresas y en el caso de que saliese adelante esta propuesta nos preguntaríamos

las dos tendrán las empleadas de hogar derecho a esta medida qué pasa con las familias migrantes

para quienes están multiempleadas bueno en cualquier caso repetimos por qué se insiste en ligar

y creemos que lo podemos aclarar y es que

es que ustedes construyen sobre la idea sobre una idea sus propuestas y es que hay ciudadanía de primera y ciudadanía de segunda por eso ni siquiera se plantean el cheque haurreskolak como una deducción ligada a la renta

mercado que por pura lógica economicista antepone los beneficios empresariales al derecho al cuidado baina gainera horrek

nuestra propuesta siempre ha sido clara y yo creo que aquí la compartimos con el resto de grupos implantar la gratuidad en la oferta de cero a tres años reforzar sus plantillas aumentar las plazas atendiendo a la demanda por comarcas y a la necesidad de conciliación y abaratar paulatinamente el coste hasta implementar la gratuidad

y por no alargarlo os comentaré el sentido de nuestro voto no hemos hecho enmienda

vamos a votar en contra de la iniciativa del grupo pp ciudadanos porque para nosotras supone una mercantilización del cuidado y un control más sobre la conciliación

y porque va contra la necesidad de garantizar los cuidados y poner las vidas en el centro este eslogan que yo creo que ya compartimos todas gure ustez

no vemos ningún elemento adicional hemos visto también

pero si su apuesta es realmente reforzar el consorcio haurreskolak pues les animamos a hacerlo menos texto y más refuerzo pero de verdad

por sumarme a la panoplia amplia de reconocimientos que el señor arrese ha hecho a toda la comunidad educativa

y a completarla añadiendo el reconocimiento a las familias

que me parece que han sido las que más han sufrido en esta tema y las que tienen un mérito indudable al respecto

he constatado que todos estamos a favor de la gratuidad de la educación infantil

la pregunta es cómo lo hacemos por qué no está funcionando

y dice que está aprobado y que la culpa es del gobierno por no ponerlo en marcha el gobierno no ha dicho nada al respecto

convendría decir algo bueno si estamos todos de acuerdo

en la que nosotros hubiéramos estado dispuestos a cuestionar el tema de haurreskolak porque efectivamente

creo que tiempo pero bueno efectivamente el origen lo que hay debajo de nuestra propuesta sin duda alguna es el tema de la igualdad de oportunidades

y es verdad que nuestra propuesta incluye esa gratuidad para todos los niños

sí porque pensamos que no hay por qué discriminarles y que al final efectivamente no se trata de que nadie haga negocio como se ha dicho aquí porque se han defendido desde modelos es decir poco menos que han convertido el en una especie de defensa del modelo heteropatriarcal

llevar a los niños a la guardería sin que esto les cueste nada

y claro yo no sé si no sé si se han dado cuenta de que en nuestra propuesta la palabra clave es cómo el cheque haurreskolak yo reconozco que tiene inconvenientes algunos los han mencionado aquí y llevan razón es cierto cómo solucionamos el tema de la gente

pero es una propuesta y repito décimos cómo y podíamos haber propuesto otras estamos esperando otras alternativas nosotros hemos hecho el esfuerzo de proponer una idea

pero bueno que efectivamente repito es una herramienta más como cualquier otra claro

y tampoco nos parece suficiente el planteamiento de pnv soe con las palabras de siempre apostar reforzar

nos gustaría un mayor compromiso nos parece que más en un tema como este en el que parece que toda la cámara está de acuerdo creo que se merece un mayor compromiso

a todas las familias vascas que tienen están en esta situación y es que efectivamente

pero espero que tengamos oportunidad de hacerlo pronto porque parece que hay una voluntad clara por parte de todo el mundo al respecto muchas gracias

rodríguez andreari refuerzos en las haurreskolak el año pasado

presupuestos del dos mil veintiuno con dos coma cinco millónes más para las haurreskolak y al señor gil el gobierno no ha hecho nada y el señor arrese también lo ha mencionado en bi mila hemezortzi se llegó a un acuerdo es cierto en el que se decía haurreskolak partzuergoaren doakotasunaren bidean lehen urrats gisa eta progresibotasunean sakontzeko